buenos días gracias presidenta sobre esta cuestión hemos debatido en varios ocasiones en los últimos meses y es posible que no diga nada novedoso

sobre esta cuestión pero sí que me gustaría reiterar los argumentos que hemos explicado durante todos estos meses

una cuestión y es que en nuestra opinión si todos los partidos políticos presentes

tuvieran la misma actitud que upyd

tienen representación el asunto de treviño se resolvería en cuatro días esta es la cuestión y creo que este es el resumen

upyd si todos los partidos políticos defendieran lo mismo que defiende upyd en esta cuestión treviño formaría parte de álava porque nos parece lo más razonable lo más lógico y lo que el sentido común nos dice a todos nosotros esto es lo que nosotros hemos venido defendiendo

en los últimos tiempos ya el día veinticuatro de junio del mismo año dos mil trece hicimos una rueda de prensa el coordinador de upyd

dijimos claramente que lo más razonable lo más lógico lo que dice el sentido común es que treviño forme parte de álava por razones de eficiencia y por razones de eficacia esto es lo importante lo importante son los derechos de los ciudadanos y no los derechos de los territorios de hecho

no tienen derechos por lo tanto lo importante es defender los intereses de los ciudadanos y también en este caso defender los intereses de los ciudadanos de treviño

han reiterado una y otra vez que quieren formar parte de álava para recibir mejores servicios ya digo por razones de eficacia y por razones

esto nosotros lo hemos defendido en este parlamento y lo hemos defendido en un lugar donde ningún otro partido político ha osado a hacerlo en concreto en la diputación de burgos hace unos meses upyd se quedó defendiendo la incorporación de treviño en álava nada menos que en la diputación de burgos razón por la cual recibimos no solamente reproches sino incluso insultos por parte

de esa diputación por lo tanto nos parece razonable que treviño forme parte de álava es lo más sensato

de aquí a unos meses o de aquí a unos años lo que décimos nosotros es que lo que se ha planteado no es lo más correcto

qué es exactamente lo que dice el estatuto de castilla y león por lo tanto nosotros instamos

en castilla y león a modificar el estatuto de esa comunidad autónoma para hacer posible lo que nosotros creo que compartimos que treviño forme

nosotros siempre defendemos posturas y posicionamientos políticos que tratan de defender los intereses de los ciudadanos para ganar en eficacia y para ganar en eficiencia

por eso defendemos la reforma del estado autonómico por eso defendemos la reforma de la ley de territorios históricos por eso defendemos la supresión

la fusión de los municipios más pequeños todas esas medidas tienen un objetivo que los ciudadanos allá donde vivan reciban los mejores

y en conclusión defendemos creo en este parlamento de manera unánime aunque seguramente por motivos distintos que treviño se incorpore a álava

defiendan esto mismo ustedes en burgos y en castilla y león modifiquen el estatuto de castilla y león

de los diputados y respeten la legalidad vigente para intentar cambiarla eso sí aquí en castilla y león y en el congreso de los diputados por lo tanto

fórmula empleada la fórmula que ustedes han elegido en nuestra opinión no es la correcta y por eso abstenido en todo caso en cuanto haya una mayoría política tanto en castilla y león como en españa distinta a la actual será posible que treviño se incorpore a álava e insisto en la idea si todos los partidos políticos de este parlamento tuvieran la misma actitud que upyd en todos los lugares donde tienen representación treviño se incorporaría en cuatro días el problema ya digo es que la fórmula que ustedes han empleado no es la más correcta porque al fin y al cabo vulnera el estatuto de castilla y león cambien ese estatuto nosotros en cuanto tengamos representamos podríamos apoyarles en eso

egun on buenos días señora presidenta señorías señor lehendakari consejeros del gobierno en relación con esta

que se acaba de aprobar por parte de la cámara a la que nosotros nos hemos abstenido

de ley que ahora se ha aprobado dimos allí nuestros argumentos de por qué no entendíamos que esta fórmula fuera la indicada para desbloquear la situación

nos abstuvimos en aquella oportunidad pues también lo hacemos ahora también lo manifestamos en la comisión parlamentaria que aprobó el dictamen que hoy se ha resuelto definitivamente

en relación con treviño ya lo hemos dicho pero lo diré una vez más en esta explicación de voto por un lado es preciso definir la posición política y de asunción de la cuestión de integración en álava también es necesario abordar qué pasos jurídicos e institucionales defendemos y entendemos que se debieran dar en relación con el camino hacia la integración y en tercer lugar es conveniente la iniciativa que los proponentes impulsaron

que nosotros tenemos que nos han llevado a la abstención treviño es esencialmente álava así lo consideramos

que lo que debe de ser también es administrativamente álava lo antes posible porque lo que es seguro es que treviño antes o después será álava eso lo sabemos todos un anacronismo histórico y un ámbito incoherente

de las relaciones instituciones administrados no se sostiene más que fundamentado en prejuicios políticos y en actitudes cerradas discrepamos abiertamente

en relación con el análisis de la integración de treviño en álava y seguiremos defendiendo lo que el sentido

el asunto del enclave no es un tema de nacionalismos ni de obsesiones de propietarios

los vínculos culturales y familiares y las necesidades administrativas se podría decir que un noventa por ciento de los alaveses tenemos vínculos de parentesco de vecindad de origen de amistad con treviño

estamos cansados de esa actitud hostil y cerrada que para lo único que sirve es para dar argumentos gratis a los enemigos de la normalidad y del sentido común

que treviño sea álava prefieren seguir enarbolando las banderas infinitas del agravio el segundo planteamiento de referencia es que sería necesario un gran acuerdo lo que hemos defendido lo que nosotros entendemos lo hemos hecho también en trabajos de la ponencia en relación con

racionalidad administrativa y de la objetividad territorial hoy en el siglo veintiuno un gran acuerdo que no deje ganadores ni perdedores y que no haga que determinados mandatarios se sientan protagonistas de una cesión territorial que no sabría explicar por ello nosotros seguimos pensando que en el marco del acuerdo general deben ser las cortes y en este caso debe ser el senado quien podría hacer esa cámara a veces

adquiriría cierto valor si tomase decisiones que afectasen a los ciudadanos para bien que desbloqueasen conflictos históricos y que procurase una administración más equilibrada y eficaz retomar los trabajos de esa ponencia que la ponencia del senado cerró en falso

yo creo que sería una buena posibilidad también el seguir trabajando en el desarrollo

sería algo que entenderíamos como lógico en el marco de trabajo de las cortes generales pero en cualquier caso trabajar por ese desbloqueo porque no haya perdedores ni vencedores en relación con esa cuestión y finalmente

sobre la vía establecida por los proponentes en el parlamento vasco a través de la cual se ha aprobado lo que se ha aprobado con esta iniciativa para nosotros

el hecho de que una comunidad autónoma euskadi desarrolle e impulse una iniciativa para modificar el estatuto de autonomía de otra vecina castilla y león hace que las reformas estatutarias puedan producirse

multilateral a los vascos no nos haría ninguna gracia que riojanos o cantabros por poner un ejemplo acudiesen

o de nuestro concierto sería injusto y no tendría ningún sentido político y sobre todo ninguna proporcionalidad institucional por eso nos hemos abstenido por ello la vía utilizada independientemente de su recorrido para nosotros es desacertada

nuestro lehendakari habla siempre de bilateralidad en las relaciones país vasco estado y sin embargo con esta iniciativa planteada se contradice la cuestión de la bilateralidad al no reconocer para los demás esa misma postura si el país vasco pide a las cortes la reforma la legalidad de castilla y león ya estaríamos de

para otros lo que correctamente reclama para el país otros eso les da igual

un neocentralismo vasco en cualquier caso desde la defensa de la foralidad no nos podemos plegar a esta vía legislativa muchas gracias

presidenta señorías el grupo

socialista a petición de los alcaldes del condado de treviño en representación de sus municipios nos solicitaron que pudiéramos tramitar la

propuesta de una ley en cortes generales para resolver ellos persiguen desde hace muchísimo tiempo que es la integración de treviño en álava una integración que en álava cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas con el apoyo de todas las instituciones y que por lo tanto goza de un altísimo consenso aunque luego haya

en qué posición colocarse pero en cualquier caso durante muchos años se ha reiterado una manifestación muy unánime en álava de que esto fuera así e igualmente en este parlamento cuando ha sido tratado a lo largo de la reciente historia este asunto

pronunciamiento un altísimo consenso a este respecto esto además se hace en un momento

la propuesta tiene una dosis de voluntad positiva tremenda se hace en el marco

se hace utilizando los recursos y las figuras jurídicas que permiten iniciar se hace en ausencia de crispación se hace con razonamientos por parte de quienes lo proponen y por lo tanto están haciendo un uso racional y lógico del que todos nos debiéramos de felicitar que es

para en sus márgenes de actuación política poder llevar una iniciativa que resuelva este asunto es más yo diría que hay que dar la enhorabuena a quienes han apostado por esta iniciativa porque lo único que han hecho ha sido interpretar la ley para hacer un planteamiento político un asunto que está bloqueado desde hace décadas yo creo que tan legítimo como que álava quiera o mejor dicho tan legítimo como que el condado de treviño quiera ser tan legítimo como que álava quiera que el condado de treviño sea álava tan legítimo como que euskadi quiera que el condado de treviño sea álava es igual de legítimo que la

o que castilla león quiera también que sea burgos o quiera que sea castilla león y precisamente esas legitimidades que están dentro de la política democrática

a un bloqueo es ese bloqueo el que se pretende resolver de una forma absolutamente democrática absolutamente institucional y con plenas garantías jurídicas más o menos a un órgano que puede arbitrar en este caso que son las cortes generales que pueden tomar en consideración una propuesta de ley para hacerla realidad si así la mayoría de esa institución lo considera que aprovechando la propia ley se resuelva definitivamente esto en el único sitio donde se puede resolver

como todo el mundo sabe ha llevado permanentemente a un bloqueo por lo tanto volver a plantear figuras de resolución de este asunto que ya han sido planteadas con anterioridad que ya han sido bloqueadas con anterioridad que no han llevado a ningún sitio o poder plantear al calor de alguna mala ley como la que aquí se ha invocado que es ahí donde hay que resolver el problema del enclave de treviño no es nada más que dar patadas al aire

no es nada más que con la boca grande decir que treviño es álava pero con la pequeña poner las dificultades y bueno yo espero que esta actuación de este parlamento que defenderemos en las cortes generales esta

de facilitar en esta cámara que se lleve adelante esta propuesta a las cortes generales para que se haga esta ley tome su consideración en esas cortes generales

lo mejor para la democracia es que cuando se planteen objetivos democráticos y perfectamente legales estos sean observados con todo mimo y con todo celo sería malo cualquier portazo antes de haber tratado con la importancia y con el respeto que se merece este proyecto lo digo porque creo que ya

al respecto creo que las cortes generales deben de tomar muy en cuenta a este parlamento y lo que este parlamento porta como propuesta para que se resuelva
la situación de treviño y por lo tanto los socialistas estamos muy satisfechos de este acto democrático y lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias muchas gracias eskerrik asko

del voto de mi grupo hoy ha sido lógicamente

tanto en el pleno de admisión a trámite de esta iniciativa como en el debate en comisión del dictamen se trata por nuestra parte de evidenciar una vez más la posición histórica de mi formación política respecto del enclave posición sostenida institucionalmente sino también socialmente señorías la aprobación en esta sesión del dictamen de la comisión de instituciones seguridad y justicia para nuestro grupo supone

como ya hemos manifestado en otras ocasiones dar cauce a una nueva vía de posible solución del contencioso habida cuenta además de que las hasta ahora ensayadas incluida la falsa propuesta

de propiciar su resolución a través de la reciente ley de sostenibilidad y racionalización de la administración local han impedido a treviñeses y treviñesas cualquier posibilidad de integración el álava

que este nuevo camino puede ser la solución jurídica y si hay voluntad también la solución política para que la población treviñesa encuentre por fin el cauce adecuado para ver cumplidas sus ansias mayoritarias y reiteradamente expresadas de pertenencia

en segundo lugar hacer nuestro como parlamento máxima institución del país ese sentir mayoritario

expresado de forma impecable y sin ningún voto en contra por sus dos ayuntamientos y en tercer lugar

si la iniciativa prospera que la lógica se imponga en la prestación de servicios a su población que como todo el mundo sabe vive

y tan solo a diez de gasteiz señorías esta cámara

fundamental en la posible resolución de este conflicto quedamos ahora expectantes ante la posición que vayan a adoptar

de las mismas formaciones políticas de este parlamento en las cortes generales yo mi grupo ya podemos adelantar el voto favorable de nuestro grupo parlamentario en el congreso y a pesar

y la contraria en madrid para nosotros para la democracia

no sé señorías si todos los grupos de esta cámara pueden comprometer también como nosotros el apoyo a esta iniciativa en madrid visto lo visto desgraciadamente parece que no va a ser así besterik ez

presidenta señorías de nuevo estamos en este parlamento tratando el cierre o la

de la central nuclear de santa maría de garoña es cierto que los argumentos para el cierre de la central nuclear de santa maría de garoña

expuestos hace muchos años ha sido un anhelo de la sociedad alavesa y de la sociedad vasca mayoritariamente el cierre de esta central había un compromiso del gobierno anterior del gobierno socialista

el consejo de ministros del gobierno socialista dejó la central nuclear de santa maría de garoña cerrada para el mes de junio del año dos mil trece y efectivamente en esa posición política se

hasta que el nuevo gobierno el gobierno del señor rajoy el gobierno del partido popular tomó la decisión de hacer todo lo que estuviera en su mano y no en su mano para la reapertura de la central nuclear de santa maría de garoña por lo tanto no son

a esta tribuna hoy los que han hecho que hagamos esta

sino la necesidad de volver a reafirmar desde este parlamento como máxima representación de la sociedad vasca negativa a esa reapertura la petición de que se mantenga su cierre la exigencia de que se haga el desmantelamiento y

es que de nuevo haga una manifestación solemne mayoritaria contra

una reapertura que proviene de un empecinamiento del gobierno del partido popular que atendería a dos características la primera la soberbia y la segunda el ridículo es bastante ridícula

que está implorando a nuclenor de todas las maneras posibles que abra esa central nuclear todo el mundo sabe que la posición de nuclenor para

la central nuclear de santa maría de garoña no se debía a una posición de carácter ecologista o a una posición

a la nuclear sino a que la capacidad de seguir explotándola con un lucro con un rendimiento económico generoso se estaba reduciendo

había aprobado una nueva fiscalidad para la energía nuclear que gravaba aproximadamente en ciento cincuenta millónes de euros la explotación de esa central

una vuelta de tuerca en la seguridad en las instituciones europeas y las exigencias de seguridad para la explotación de la energía nuclear habían aumentado con lo cual también llevaba

para cumplir con esas nuevas exigencias de seguridad nuclenor no se puso a los riesgos o a los problemas o a las peticiones o necesidades de la energía

querencias de los ciudadanos sobre los tipos de energía etcétera sino que estaba ante una evidencia la explotación de la central nuclear no les resultaba rentable y

por retirarse desde entonces el gobierno no sabemos a cuantas trampas habrá acudido porque nos tememos que a unas cuantas ya que sin ningún acto político

cuestiones parece que permanentemente le está ofreciendo a nuclenor la vuelva a abrir claro si nuclenor tiene un problema de exigencia en el sentido de la seguridad que le cuesta un dinero y tiene un problema de exigencia en la política fiscal y sin embargo

a hacer alguna trampa política para facilitarle

ni el desembolso de la seguridad porque de lo contrario como he dicho antes simplemente rallando no rallando estaría inmerso en el más absoluto de los ridículos políticos pero bueno probablemente al partido popular el ridículo le viene al gobierno del partido popular el ridículo le viene de su soberbia política una soberbia en la que sabe dos cosas

la segunda que ya se ha cumplido con la vida útil de esta central que además no aporta nada a las necesidades energéticas y que además es mentira casi todo lo que se dice entorno a ella porque además de no

esta energía por la ciudadanía y vaya empeño en querer imponer a los ciudadanos todo lo que no queremos además de eso es una energía que

pero que sin embargo la ciudadanía nunca los ve porque lo que termina consumiendo la ciudadanía con independencia de la fuente por la que le venga cara cada vez más cara y con unas subidas absolutamente abusivas como la que hemos sufrido recientemente por lo tanto estamos como digo ante un acto de soberbia estamos ante un acto de ridículo del gobierno de españa con su política energética que este parlamento tiene la obligación de volver a contestar

hace escasas semanas en este mismo año que ya está preparando incluso previsiblemente se iba a hacer

pleno del parlamento vasco en unas fechas en las que el consejo de ministros ya iba a firmar la autorización para la reapertura de la central nuclear no parece que eso se haya producido todavía pero en cualquier caso parece que al caer precisamente por eso porque de nuevo está esta vuelta

sobre la política energética y la política nuclear del gobierno de españa es por lo que este parlamento tiene que volver a posicionarse nosotros lamentamos mucho que haya un gobierno tan insensible tan insensible que ya no es que no escuche a nacionalistas a socialistas a ecologistas

sino que no escucha ni a su propio partido el señor maroto el alcalde de vitoria aquí hoy presente

parece ser que le pedía al ministro soria hace unos pocos días que no

por ese camino más allá de que en la intimidad ustedes hablen es evidente que no le hace ningún caso y yo no sé si como consejo le podría decir que igual si se hace socio del numancia pues desensibilizaría al señor soria porque es que

la que está planteando el gobierno de españa para abrir en contra absolutamente de todo de la seguridad de la economía de la ciudadanía del futuro del progreso absolutamente en contra de todo querer empecinarse querer imponer la reapertura de esta central nuclear por lo tanto esta es la razón por la que venimos a este con esta iniciativa que presentamos en su día que ha tenido el apoyo por parte del grupo nacionalista y del grupo bildu y que también ha tenido la aportación por parte del grupo bildu de una serie de planteamientos que están recogidos en esa enmienda transaccional que hemos firmado los tres grupos en la que se vuelve a exigir el cierre de la central nuclear y en la que además se plantean una serie de acciones una serie de encargos incluido al propio gobierno vasco para que se hable con endesa se hable con iberdrola

se aclaren cuáles son las razones por las que también ellos están en esta

la central nuclear de santa maría de garoña está más que sentenciada creo que todo el mundo comparte que no es rentable económicamente ha cumplido su vida útil no goza de las exigencias es contraria a los intereses de los ciudadanos no apuesta por el futuro hoy hay una posición en nuestra sociedad bastante extendida de que las energías renovables son las que tienen que ir sucediendo a las energías fósiles

japón tiene un programa de cierre de las centrales nucleares que finaliza en el año dos mil treinta alemania tiene un programa

españa tenía un programa también de cierre de las centrales nucleares y de sustitución por otras energías renovables somos un país y especialmente en el país vasco

en tecnología de energías renovables somos un país que tenemos además condiciones para explotar energías renovables parece razonable

residuos de incalculable inseguridad en el tiempo de infinita inseguridad en el tiempo parece razonable que eso se vaya abandonando y que se vaya apostando por otras políticas energéticas de progreso bien todo esto parece

incumbe que no lo desea el partido popular que no lo desea el gobierno de españa y precisamente por eso cuando nuclenor no ha hecho

a la explotación de esta central sin embargo sí está el gobierno de españa insistiendo casi forzando casi obligando a que se produzca esa reapertura nosotros como he dicho creemos que esto está visto para sentencia que esa central nuclear

apostamos por que no se vuelva a abrir no tiene ningún sentido y por eso hemos traído esta iniciativa a este parlamento por eso queremos que una vez más se manifieste en contra de la reapertura

hay un altísimo consenso en esta cámara para hacerlo y espero que alguien más muestre

que no siempre la soledad es la mejor de las consejeras piense que en una sociedad hay que actuar colectivamente que cuando la mayoría puede tener razón es bueno formar parte de la mayoría y que

el pepito grillo de todos los actos políticos de ninguna institución

esas razones de cercanía a la ciudadanía esas razones de estar con la ciudadanía lleven a algún grupo político a cambiar su posición y también a apoyar esta pnl que hemos presentado los socialistas y que ya goza del respaldo y de la aportación

en su propuesta inicial para pedir la no reapertura de garoña creemos también que es el momento de apuntar a las empresas que gestionan

y endesa porque el gobierno central va a poner en sus manos la posibilidad de abrir hasta sesenta años

nuclear de garoña dos empresas multinacionales del oligopolio eléctrico dos empresas que en los últimos meses se han descolgado

iberdrola nos dice en su anuncio que de los cincuenta y uno euros de la factura mensual de un hogar medio

el resto nos dice treinta y dos euros más de la mitad de ese coste son costes ajenos al suministro eléctrico y lo dice así sin ningún problema hay que tener morro a estas alturas y hay que tener cara a estas alturas para decirle a un ciudadano

reto a cualquiera de las señorías que está aquí sentado a que explique si puede todos y cada uno de los conceptos que componen la factura

pero es que además nos mienten porque no dicen que son eso de los costes ajenos quieren apuntar como lo hace el señor galán

a las energías renovables cuando saben que es mentira que las energías renovables encarezcan la factura

pero no dicen que en eso que se llaman subvenciones medioambientales lo que son las primas al régimen especial donde desde luego está la eólica y la fotovoltaica

saben bastante porque no nos dicen que en esos costes ajenos que engorda la factura

están los costes de distribución y comercialización que han subido un cuarenta y tres por ciento en los últimos cinco años cuando la demanda

los distribuidores y comercializadores de esa energía eléctrica principalmente las empresas de unesa principalmente endesa e iberdrola que se han embolsado desde el año dos mil cinco al dos mil doce

millónes de euros porque no nos dicen que en esos costes ajenos a la factura

también está por ejemplo el coste extrapeninsular el hecho de que

y para hacer que el precio de la factura de la luz sea similar al de la península hay que pagar a las empresas que generan esa electricidad principalmente desde el año dos mil ocho

por no hablar de las subvenciones al carbón por no hablar de la moratoria nuclear por no hablar del coste de la gestión de los residuos nucleares etcétera eso es lo que estas empresas que nos mienten en los medios de comunicación llaman costes ajenos por lo tanto además de decirle al gobierno que no se puede seguir poniendo por encima de los intereses generales los intereses económicos

hay que decirle también que no se puede seguir gestionando una central nuclear de más de cuarenta años a estas empresas que única y exclusivamente buscan su beneficio económico beraz gure ekarpenak

sí gracias presidenta lo cierto es que cada vez es más difícil debatir de manera razonada

en los últimos tiempos y también en concreto en relación a este asunto de la central nuclear de garoña porque lo estamos comprobando especialmente en los últimos tiempos estamos asistiendo a un proceso que en fin está siendo

por el decretazo por el tejemaneje por la normativa ad hoc por el decreto ex profeso

un proceso que se puede definir como una especie de vodevil una

la trampa el privilegio el chantaje y la amenaza y cuando todos estos adjetivos rodean a lo que ha venido haciendo el gobierno en relación a una cuestión tan sensible y tan importante como esta pues ciertamente es complicado

determinados argumentos que se pueden compartir o no por el resto de grupos pero que en nuestra opinión son argumentos razonados y son argumentos

y están también sustentados en razones no solamente políticas sino científicas es complicado porque quizás lo más importante de todo esto ya digo ha sido

la normativa ad hoc la falta de transparencia la opacidad y todo esto que ha venido haciendo el gobierno de españa en este asunto que por otro lado es lo que caracteriza la acción del gobierno de españa en los últimos tiempos no solamente en relación a este asunto sino en relación

argumentar las razones por las cuales hemos presentado una enmienda muy parecida a la que ya presentamos hace unos meses cuando debatimos este asunto y por qué

los mismos argumentos y la misma posición política nosotros siempre hemos dicho que preferimos atenernos a las recomendaciones técnicas

y siempre hemos reclamado un debate transparente propio de una sociedad adulta que quiere saber que quiere recibir información y que quiere formarse una opinión sólida sobre la materia alejada de dogmatismos o de demagogia siempre hemos defendido un debate serio

para que el conjunto de la sociedad pueda conocer los costes y las ventajas reales de cada alternativa y a partir de ahí evidentemente tenemos nuestra opinión

el retorno digamos de la central nuclear de garoña o la puesta en marcha de la central nuclear de garoña o la utilización de la central nuclear de garoña cumpliendo

incluidas obviamente las nuevas exigencias europeas sería una solución económicamente razonable y comprensible nosotros pensamos

el actual mix energético en el actual mix energético la energía nuclear juega un papel importante y que sigue siendo por tanto necesaria en contra de lo que

que hemos recibido viene a plantear la energía nuclear sigue siendo necesaria hoy en día en españa y evidentemente las energías renovables no son suficientes esto se sabe

pero que a día de hoy la energía nuclear es necesaria nosotros pensamos que un sistema con mucha energía renovable necesita una potencia garantizada de base

los altibajos de precios y de potencia de las renovables también los picos y los valles de la demanda o los fallos de otras fuentes y ahí las nucleares cumplen

que contaminan la atmósfera y dependen de hidrocarburos o carbón importado por eso a nosotros nos parece bien conservar las nucleares que hay para ese papel fundamental siempre y cuando cumplan todas las condiciones de seguridad que sean todas y cada una de ellas también lo que dispone la normativa europea las recomendaciones europeas de los últimos tiempos y evidentemente habría que mejorar las que siguen en marcha la opción del futuro será el aumento de las energías renovables alternativas pero estas energías tienen aún costes

la energía nuclear a día de hoy sigue siendo necesaria

cumpliendo rigurosamente todos los requisitos exigidos y todas las condiciones de seguridad que sean necesarias podría en su caso seguir funcionando

si cumpliera todas las condiciones de seguridad nos parece la solución económica más razonable

y si observamos lo que ha ocurrido en españa durante los últimos meses en relación a esta cuestión no voy a hacer un resumen de lo que ha ocurrido desde

dos mil once pero lo conocen todos ustedes perfectamente bien lo último que conocemos son las intenciones del gobierno y la chapuza generalizada o el decretazo

ha tratado de presionar al gobierno para poder disfrutar de determinados beneficios y para tratar de recibir determinados privilegios

pedíamos en aquella enmienda de totalidad que ya presentamos y defendimos en junio del año pasado una enmienda que reiteramos en esta

venía a decir cuidado que puede ocurrir esto y la enmienda que hemos presentado y que defendemos hoy digamos que es una enmienda recordatoria que viene a decir efectivamente ha ocurrido lo que nosotros dijimos que no debía ocurrir

a mantener las exigencias de seguridad y por tanto todas las inversiones necesarias para que la central nuclear de santa maría de garoña pudiera si fuera el caso

actualmente paralizada haciendo respetar en todo caso y sin trampas de ningún tipo la normativa europea de seguridad y las exigencias internacionales

segundo punto es exactamente el mismo que ya defendimos hace unos meses proponíamos instamos al gobierno de españa

ad hoc para ninguna central nuclear ni aplicar la existente de forma espuria ni a realizar interpretaciones tramposas de la normativa vigente para beneficiar

particulares ni a conceder ningún tipo de beneficio fiscal personalizado a que no ceda ante ningún tipo de presión chantaje o amenaza y actuar siempre y en particular en este caso con absoluta claridad y transparencia trasladando toda la información que sea precisa tanto a la ciudadanía como a los grupos parlamentarios del congreso de los diputados precisamente

en los últimos tiempos crear normativa ad hoc asumir el chantaje opacidad falta de transparencia tanto es así que el propio incluso con el apoyo del grupo parlamentario del partido popular en el congreso de los diputados se niega incluso a que el propio ministro pueda comparecer en el congreso de los diputados para explicar este asunto

un bochorno por lo tanto no sé si nos encontramos ante un gobierno insensible como decía

ante un gobierno claramente insensible pero es que nos encontramos ante un gobierno

incapaz de hacer las cosas medianamente bien prácticamente en ninguna cuestión ha ocurrido en esta cuestión en fin

proponíamos instar pedir al gobierno a que no cree normativa ad hoc a que no haga trampas a que no asuma ningún chantaje a que no se deje chantajear

pretende hacer de ahí y por todo esto nosotros mantenemos nuestra enmienda de totalidad ya digo en su día esta enmienda venía a ser

recordatoria decíamos que el gobierno no podía hacer lo que finalmente parece ser que es lo que va a hacer

en todo caso más allá de la transaccional que ustedes han firmado nosotros votaremos nuestra enmienda de totalidad para exigir

para exigir rigor para exigir al gobierno

técnica científica etcétera esto es lo que nosotros defendemos en nuestra enmienda de totalidad que es la que votaremos gracias eskerrik asko maneiro jauna

a ver si no nos llama nadie nada en este turno gracias señora presidenta señorías señor lehendakari señores del gobierno

señor prieto ninguna novedad en su iniciativa

poco tiempo hace pocos meses que debatimos esto mismo

y que mi grupo no quiere reproducir como debate reiterativo caduco a usted señor prieto el premio nobel de física

muchas iniciativas sobre centrales nucleares que presente y mucho menos cuando el partido socialista obrero español

en sus mandatos ha sido abrir e inaugurar centrales nucleares o mantener y prorrogar la vida útil de las centrales nucleares existentes

pudieron haber cerrado garoña pudieron haber ordenado su desmantelamiento y no lo hicieron la prorrogaron cuatro años y los socialistas señor prieto abrireron e inauguraron

almaraz segundo ascó primero ascó segundo cofrentes

trillo esa es su historia la historia de los socialistas a la que una buena representación

propiciaron una ley que ampliaba más allá de los cuarenta años la vida útil de las centrales nucleares ustedes así lo hicieron en febrero de dos mil once en el senado se aprobó una enmienda a su ley a la ley

que permitía ampliar la vida útil de las centrales nucleares más allá de los cuarenta años si así lo autoriza el consejo de seguridad nuclear esa es su trayectoria desde luego

en el que nosotros nos movemos el cumplimiento de la ley

y las exigencias de seguridad y de operatividad que el consejo de seguridad nuclear establezca y exija nos sabemos qué van a hacer endesa e iberdrola accionistas al cincuenta por ciento de nuclenor

sí sabemos que para cualquier decisión que tomen en relación con la reapertura de la central deberán de cumplir los requisitos establecidos en las normas aprobados

como ya le he dicho antes y por los requisitos que sobre la seguridad del suministro energético la optimización de los costes energéticos y la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero deban de tenerse en cuenta en la máxima seguridad por el citado consejo de seguridad nuclear la política energética del gobierno de españa se basa en la existencia de un mix diversificado equilibrado y sostenible tanto desde un punto de vista medioambiental como económico

con todas las fuentes energéticas y todas las capacidades disponibles y hoy para que eso sea así el gobierno de españa considera que en las actuales circunstancias económicas y teniendo en cuenta que españa es uno de los estados miembros de la unión europea con una mayor dependencia energética del exterior

ninguna de las fuentes energéticas disponibles

ha tenido en el último año de su explotación efectiva una producción energética

un tercio de la energía eléctrica del consumo eléctrico de castilla y león en un año y eso señorías es mucho y eso señorías cuesta

elementos o a dos patas básicamente uno son los propietarios y otra es el consejo de seguridad

por la seguridad de la energía que se produce y de las instalaciones de este tipo que existen en nuestro país claro que aporta señor prieto claro que aporta la central bueno pues ahí están los datos da empleo directo o indirecto

a más de sesenta y tres empresas los municipios del entorno de la central han recibido en los últimos años veinticinco millónes de euros concretamente en dos mil trece fueron cuatro millónes de euros la facturación pues es de ciento noventa millónes de pesetas

algunos pretenden contraponer en este momento a lo que estamos hablando como si fueran incompatibles en relación con esa necesidad de un mix energético en este momento por darle un dato toda la instalación de energía fotovoltaica en nuestro país en españa produjo en el año dos mil once

de garoña produjo tres mil ochocientos gwh lo que ocurre es que los españoles

por los siete mil trescientos de la fotovoltaica hoy por hoy esperemos que algún día menos pero hoy por hoy exactamente dos mil setecientos cincuenta y cinco millónes de euros y por los de garoña ciento noventa millónes de euros

así estamos porque claro que la energía barata sirve para generar empleo claro que sí ya lo hemos visto en la subasta del cesur ese modelo

compañero suyo de partido que la no regulada se ha disparado gracias a esas

hasta precios de noventa euros cuando lo que cuesta producir ese tipo de energía de respaldo es de cincuenta euros por ejemplo en las de ciclo combinado y de dieciocho euros en la que produce garoña

pero el problema señor prieto el problema es que hay que encender la bombilla de los comercios todos los días hay que poner en marcha

es que nuestro sector del automóvil nuestro sistema productivo industrial la carga del móvil o del ipad que usted tiene es decir todo eso hay que ponerlo en marcha todos los días

y habrá otros que puedan permitírselo pero es que el modelo que han diseñado ustedes los socialistas ha sido que ha hecho que la tarifa en el año dos mil cuatro era una de las más baratas de europa y ahora con su sistema sea la tercera más cara es decir por detrás de chipre e irlanda que son dos islas eso tiene que ver no con el desarrollo de las energías renovables sino con que ustedes han diseñado o diseñaron el desarrollo de las energías renovables basado en primas de tal manera que el megavatio de la fotovoltaica nos cuesta trescientos setenta y cuatro euros el de la solar termoeléctrica que ustedes pusieron en marcha en dos mil diez en un campo absolutamente saturado doscientos ochenta y nueve euros la eólica noventa y uno la cogeneración

antes la producción de la que estábamos hablando eso es lo que crea o deja de crear empleo efectivamente

muy clara y con todas las garantías de lo que tiene que ser seguridad nuclear seguridad de producción en este caso cada vez que empieza el año los españoles

solo de los tipos de interés del agujero que ustedes nos han dejado ustedes hicieron experimentos para hacer energía para ricos desgraciadamente

y entre ellas de las que estamos hablando y un gobierno tiene que ser responsable y eso es lo que está haciendo efectivamente la novedad de este debate la novedad de esta iniciativa que no es la

está en las enmiendas que incluye el señor maeztu y en la transacción que efectivamente

pero en cualquier caso que parece que va a asumir es decir

o endesa por dejar de apostar por garoña y la energía de esas características y mandarle al gobierno vasco

que también a su vez exija a las empresas el cierre el desmantelamiento de la central es decir que este parlamento o que el gobierno vasco exija a nuclenor a través del señor sánchez galán o del señor brentan a que tomen medidas en contra de sus intereses empresariales

con los intereses de la producción energética que defiende el gobierno de españa eso van a tratar de hacer ustedes ya sabemos lo que va a hacer el pnv lo sabemos a la vista de lo que

que hasta ahora no ha hecho nada el partido nacionalista vasco que hasta ahora no ha hecho nada cuando está representado en alguno de los consejos de administración de algunas empresas por recordar el dato kutxabank tiene una participación estratégica

el pnv tiene mayoría absoluta en kutxabank y el señor irala representante de kutxabank

hasta la fecha no se ha actuado por parte del pnv económico

en el sentido del desmantelamiento del cierre no se ha actuado allá donde se podía actuar es decir en el seno

a través de kutxabank no se ha actuado en cualquier caso igual ahora es al señor urkullu o al consejero la señora tapia a uno de sus consejeros

esta iniciativa que ustedes van a apoyar aunque igual

el señor bilbao si ve peligrar la implantación en bizkaia de esa formidable

ejemplar también en la producción de energías renovables

en contra de la transacción con el voto particular del señor maroto muchas gracias eskerrik asko barrio jauna eusko abertzaleak taldearen

udaletxe gehienetan adostutakoari yo antes de empezar quería centrar un poco el debate porque siempre que hablamos de garoña se nos va un poco el debate por el aire y hablamos de las renovables la energía nuclear en general

de santa maría de garoña no hablamos de almaraz no hablamos de la red eléctrica no hablamos de las tarifas hablamos simplemente del cierre de una central completamente y el cierre es simplemente por motivos de seguridad es una central que está pensada para unos años que parece que se puede triplicar su duración y creo que la pnl de hoy al menos en nuestro sentido no habla de términos generales nucleares porque yo siempre he dicho

anti santa maría de garoña por qué es anti garoña por la seguridad

tomó la decisión de cesar la actividad nuclear de garoña no podía haber elegido un día mejor porque todos nos dimos cuenta de que era la inocentada

a pensar que el gobierno de madrid tenía que dar evidentemente unas ventajas supletorias para que nuclenor otra vez volviera con la actividad

normal de veinticinco años y para una duración límite de cuarenta años la central ha funcionado ya durante cuarenta y cuatro años

viven cerca de medio millón de personas y dos millónes de personas

ahora estamos todos cómodamente sentados aquí en el corazón de la ciudad de vitoria gasteiz y estamos sin darnos cuenta quizás a una distancia en línea recta de cuarenta y cuatro kilómetros y trescientos ochenta y cinco metros de garoña distancia que los vientos dominantes de la zona no tardarían en recorrer en menos de dos horas

la electricidad genera por garoña no es necesaria por dos razones en primer lugar solo suponía como se ha dicho antes ya el uno por ciento

eléctrica del estado español y en segundo lugar dada la bajada de demanda eléctrica ahora es cuando hace falta menos una sobre generación y a esto evidentemente hay que añadir

los dos factores a parte de la seguridad que demuestran que garoña no es indispensable en ningún sistema eléctrica no es necesaria su aportación de electricidad porque ha bajado la demanda

de coste ni para los clientes ni para la industria la conclusión de todo esto es que el único interés de garoña es el de los accionistas de su empresa explotadora y esto no es nada lícito

de varios miles de personas miles de hectáreas de cultivos e incluso de ciudades cercanas como vitoria gasteiz entendemos que una empresa privada puede jugar con cualquier elemento

es que una parte de su negocio afecte o se base en la seguridad de las personas que

cuantificar en varios cientos de miles como el pnv no se fía evidentemente de la interlocución del gobierno de madrid en el asunto de garoña

presentaba tres preguntas ante la comisión europea y también los razonamientos previos que son los siguientes

presenta un riesgo de inundación muy alto en caso de rotura de las presas cercanas y tiene deficiencias en la custodia y la protección del combustible gastado en caso de pérdida de temas de refrigeración

con riesgo de explosión en la contención del reactor y finalmente se detectaron deficiencias también cómo no en los planes de emergencia ante una posible catástrofe nuclear en consecuencia las inversiones que requiere dicho programa de mejoras técnicas no parece coherentes con una prorroga explotación con los cuarenta en instalación abierta para veinticinco ni con las capacidades

de generación eléctrica aquí están las preguntas que realizaba izaskun bilbao

en primer lugar le preguntaba ha sido informada la comisión europea del proceso emprendido para permitir la reapertura de garoña en segundo lugar preguntaba si dispone la comisión europea

a las exigencias técnicas en vigor tras la catástrofe de fukushima y por último

a la vista de los dos disponibles la reapertura de esta central nosotros apoyamos la enmienda transaccional de los socialistas y de bildu

estamos hablando de una central vieja obsoleta anticuada peligrosa innecesaria amenazadora caduca

obsoleta arcaica y pongan ustedes todos los sinónimos que

que ha envejecido la central y que su gran amenaza es la amenaza de la seguridad en todos sus alrededores

con objeto de este mismo debate en esta cámara le expliqué y hoy le vuelvo a reiterar

algo que viene de la naturaleza y que obligadamente estamos necesitados de su preservación sino que

si usted quiere ser pronuclear si usted defiende la energía nuclear como energía de futuro energía de progreso etcétera pues

esa opción explique sus bondades pero no confunda las cosas

aquí estamos ante un pronunciamiento en el que este parlamento en representación de la sociedad vasca muy especialmente de la sociedad alavesa por una serie de consideraciones que se han expuesto

quiere el cierre de esta central nuclear y quiere seguir manteniendo

actividad energética que le suministre a sus necesidades pero con otras fuentes de energía mire hay una cosa que el señor barrio no la ha tenido en cuenta en su exposición porque como venía con el discurso demasiado hecho de antemano

la necesidad de la energía nuclear para que no se cierren los comercios para que no se cierren las industrias oiga no se ha enterado usted que llevamos un año y pico

de santa maría de garoña me quiere decir cuántos comercios

han cerrado por la ausencia de energía para sus bombillas y para sus actividades industriales

los papeles nuclenor eso además ha sido histórico aquí y en otras instituciones pero es que a veces no lo revisa

sin un poquito de rigor pues le lleva a estos planteamientos tan absurdos

si no funciona garoña cuando garoña no está funcionando y no ha pasado absolutamente nada porque su energía no es necesaria y porque además su energía no es querida

desde el punto de vista energético y tampoco desde el punto de vista económico mire usted ha tenido mucho empeño en focalizar en mí su intervención y en políticas del partido socialista o de los gobiernos socialistas anteriores oiga no empeñe tanto tiempo en mí para terminar su intervención aquí con una frase

que por cierto es más que la voz de un parlamentario es la voz de un servidor público de un representante institucional que tiene eco en unas fronteras más amplias

el señor maroto es un insensato se ha pasado a los que quieren cerrar la central nuclear qué pasa que el señor maroto quiere que fracase la actividad económica y comercial

al fin y al cabo yo ya tengo una posición política tomada una posición política definida que la expreso que efectivamente es contraria a la suya pero ya ve que también entre sus filas

que están absolutamente en contra porque la vida es como la realidad la va describiendo no le entretenga

al señor barrio porque luego como no me escucha me contesta con escritos de meses anteriores

y sin necesidad de tenerlo de antemano escrito

nosotros el partido socialista los socialistas en general aquí y en otros lugares en su día

la energía nuclear al progreso ha tenido su afectación a la modernización lo que ocurre es que el progreso y la modernización aunque usted no se haya enterado es renovable también es modificable

económicas o de otro tipo sino también por necesidades culturales por necesidades sociales por cómo evoluciona la sociedad pero efectivamente

como no puede ser de otra forma cualquier acción que en su día cualquier política que en su día se haya llevado a cabo y que tenga una afección y una afectación a la sociedad o a otro tipo de riesgos tiene sus servidumbres

la sociedad alavesa la sociedad vasca con la ubicación de la central nuclear de santa maría de garoña ya ha contribuido a la energía nuclear

y por lo tanto cuando ha expirado esa vida útil

contribución y nuestra aportación ahora quítenosla porque hay otras energías alternativas y porque hay unos riesgos de seguridad que en el tiempo son

termino con una cosa mire lo más importante lo que a mí me parece que sería lo mejor que podría hacer usted en el día de hoy en el caso de que lo sepa

explíquenos cómo es posible que cuando nuclenor

también va para el gobierno de españa y también se las haremos llegar a todos ellos

de no seguir explotando la central nuclear de santa maría de garoña

en inversiones de seguridad y otro coste de ciento cincuenta millónes de euros en política fiscal explíquenos
incluso con la cuenta de explotación que usted ha presentando aquí prieto jauna amaitu mesedez ahora termino señora presidenta
es que si no no termino de hacerle la pregunta cómo es posible que sin haber

un pronunciamiento público sobre que no hace falta esa seguridad o que no se va a condonar esa política fiscal cómo es posible que hoy se esté hablando de reapertura

sobre ese asunto trescientos millónes de euros están volando por el camino en seguridad

están jugando con ello no están aclarando qué es lo que están haciendo y esto es lo que tendría que explicar

baino gezur handi bat da porque el señor barrio

los costes medioambientales de la energía nuclear por qué es en el año dos mil trece cuando se establece

al combustible nuclear cuando garoña dice que ya le deja de ser rentable porque hasta entonces y muchos años anteriormente hemos estado pagando entre toda la ciudadanía los costes de la gestión de los residuos nucleares pero además decir todavía hoy cuando está cerrada la central que es necesaria para la

energética cuando no ha pasado absolutamente nada en el sistema

sobredimensionado en producción no ha pasado absolutamente nada con el cierre de garoña decir que es necesario es ir en contra de lo que dicen los datos y lo que dice

hablaba usted de generación de empleo el pasar de un modelo de producción centralizada

productores de energía sobre todo basados en la nuclear y en los combustibles fósiles a un modelo energético que es posible de generación distribuida renovable

lo que supondría en innovación y en desarrollo lo que supondría

en desarrollo industrial no lo consiguen

el problema es ese el problema es la apuesta que han hecho durante muchos años cinco grandes empresas del oligopolio eléctrico donde están

después por el carbón y posteriormente por el gas natural y tienen que rentabilizar esas inversiones y en estos momentos de bajada de la demanda eléctrica les sobra la producción renovable y sobre todo la pequeña

y lo que no me llego a explicar es como le extraña a usted tanto que haya una apelación directa a las empresas en definitiva van a ser ellas las que van a tener que decidir si piden

de una central nuclear como garoña que se hizo para veinticinco funcionó cuarenta y uno y pueda funcionar hasta los sesenta años pero lo que más me extraña todavía es que usted se sorprenda cuando en el ayuntamiento de vitoria por unanimidad salió esa misma apelación en vez de decir al gobierno vasco se decía al ayuntamiento de vitoria y en vez de decir trasladar

pero salió con los votos favorables del partido popular y del alcalde del partido popular que está sentado a su lado salió esa misma moción con ese mismo texto eta bukatzeko bakarrik

es fácil contestarle señor prieto usted ahora pues adopta una nueva pose

electoralista que no es coherente con lo que han sido sus actuaciones no es coherente

los reyes de la energía nuclear en españa ustedes han sido los que han abierto todas las centrales nucleares que le he comentado yo antes y ahí siguen y ustedes han sido quienes han prorrogado la vida útil de santa maria de garoña y quienes han provocado que hoy estemos teniendo el debate que estemos que sea la decisión

que nuclenor tenga que adoptar esas empresas deberán

deberán de cumplir los requerimientos del y los dictámenes del consejo de seguridad nuclear que ya se ha pronunciado reiteradas

no hay problemas de seguridad ha habido problemas de otro tipo así que en ese sentido esas empresas deberán de tomar esa decisión pero vuelvo a decir

electoral parece que conveniente para ustedes pero no responsable y sobre todo

la postura del gobierno de españa la defiendo

entiende en relación con la política energética que se basa en la existencia de un mix de diversificado equilibrado sostenible

y como económico en é que se cuente con todas las fuentes energéticas con todas las capacidades disponibles

teniendo en cuenta que españa es uno de los miembros de la unión europea con mayor dependencia energética del exterior no puede dejar de utilizar o infrautilizar

y legales eso es lo que yo he dicho y eso es lo que yo he defendido y esa es mí posición en relación

con lo que le he planteado antes yo no me invento nada ni a mí me han dado ningún papel yo defiendo lo mismo

en coherencia con lo que ha sido el desarrollo y los debates de seguridad tecnológica energética en relación con la producción

de energía yo estoy en relación de una instancia que tengo que explicar a usted usted

pero qué hacen sus colegas entonces en madrid qué hacen sus colegas en madrid en relación con las preguntas con la capacidad de control

estará a otros debates igual a este que efectivamente es un debate

a este debate él está en otros debates yo le respeto y en ese sentido

en relación con estas cuestiones pero no me venga a mí a pedir responsabilidades yo le he dicho y le estoy diciendo lo mismo que le decía hace unos meses

y que todo se debe de fundamentar en la seguridad tecnológica en la seguridad energética en la legalidad existente

el consejo de seguridad nuclear y lógicamente en lo que sea la voluntad de los propietarios que hoy por hoy se mueven en la legalidad y quieren que su empresa

siga produciendo por otro lado en intereses empresariales que coinciden con los intereses generales del

sé me echan un poco en cara algunos portavoces la actitud del señor maroto

pero usted quédese con el discurso que yo hago porque ese es el discurso del grupo popular ese es el discurso hoy por hoy que entiende lo que debe ser y que respeta y que respalda la actitud

señor maeztu ninguna lección ninguna

ya conocemos la política medioambiental

de sus predecesores en el puesto su grupo parlamentario

ha condenado ninguno de los atentados cometidos contra personas y contra intereses que tenían que ver con la energía nuclear

del voto yo los que no apoyamos garoña evidentemente nunca tendremos ninguna responsabilidad en un hipotético accidente nuclear yo quería dirigirme a quienes van a apoyar la reapertura de garona y decirles que si

pero también habría una responsabilidad compartida por parte del gobierno de madrid que ha apoyado o que está apoyando esa posible reapertura y también por parte de todos los políticos parlamentarios que con su voto puede que posibilitaran la reapertura de una central insegura y

no he dicho el tema nuclear porque todos creo que hasta ahí ya se sobreentiende

ninguna central nuclear en euskadi por la densidad de población de este país y por miles de motivos más es decir yo he querido separar garoña porque creo que el tema principal es la seguridad de garoña pero estaba sobreentendido que creo que

imaginar en cualquier punto de euskadi en el siglo veintiuno una nueva central

dos imágenes decía mcluhan que una imagen vale más que mil palabras y yo

hablar de las tripas hablar de corazón ponernos en plan catastrofista pero evidentemente a la vista de lo que se pretende que son algo así como

podemos permitirnos ver la bola de cristal y ver que puede que todo no saliera bien y puede que hubiera cierto entre comillas

y creo que a nadie le gustaría ver en cualquier rincón de álava que se repitieran aquellas atroces escenas que vimos

de miles de hectáreas que van a estar décadas sin poder cultivar

a su casa y esas dos imágenes como se imaginan quienes van a votar a favor de garoña son simplemente chernobyl

sí gracias presidenta nosotros hace mes y medio realizamos una interpelación al consejero

biocruces y los pasos que iba a dar el departamento para conseguir

logre la acreditación del instituto carlos tercero y fue una forma digamos de presionar pero también de ayudar al consejero aunque él no se lo crea yyudar al consejero ayudar al gobierno para que entre todos

logre la acreditación en ese sentido aunque el señor consejero no se lo crea era una interpelación constructiva una interpelación en positivo del mismo modo que la moción que hemos presentado era también y sigue siendo una moción constructiva porque es obvio que a día de hoy este instituto no ha logrado la acreditación a pesar de que el propio consejero hace unos meses dijo que se lograría la acreditación durante el año dos mil trece ciertamente ese plazo no se ha cumplido y por lo tanto se trata de que se tomen las medidas necesarias para que esa acreditación se logre

ya digo que es un deseo mayoritario es un deseo unánime de todos los grupos parlamentarios y estamos seguros también que el consejero por supuesto quiere que así sea que el propio gobierno quiere que así sea lo que el gobierno y el señor consejero tiene que comprender especialmente este señor consejero tiene que comprender usted que los grupos parlamentarios de la oposición estamos para interpelar y para preguntar al gobierno

en los objetivos que todos compartimos por lo tanto yo le recomiendo señor consejero para mañana mismo empezar a que usted tome una actitud positiva en relación a las preguntas

que se le realizan porque da la sensación que usted a veces se pone demasiado a la defensiva y piensa que el deseo de los grupos parlamentarios es torpedear la acción del gobierno y no es así en absoluto no fue así cuando presentamos esta interpelación

y ni siquiera es así cuando hemos llegado a una transaccional con el partido popular y con el partido socialista de euskadi fíjese usted señor consejero una transaccional que ha incorporado lo que el señor

me pidió ayer por la tarde que incorporase y que sin embargo no ha facilitado la firma

del grupo nacionalistas vascos por lo tanto presentamos una interpelación presentamos una moción y presentamos ahora firmada

el grupo popular y el grupo socialista qué es lo que dice esta transaccional proponemos instar la departamento de salud a tomar todas las medidas necesarias para subsanar

todos los incumplimientos y aplicar todas las recomendaciones recogidas en el informe de visita previa realizado por el instituto carlos tercero en relación al instituto de investigación biocruces

con garantías dicha acreditación durante el primer trimestre de dos mil catorce y solicita la comparecencia del propio consejero de la directora de investigación e innovación sanitaria y del director de biocruces a fin de que expliquen las medidas puestas en marcha

a esa fecha veintiocho de febrero para que el instituto pueda cumplir todos los requisitos necesarios para su acreditación en principio esta transaccional no hablaba de incumplimientos ni hablaba de recomendaciones sino que hablaba de deficiencias

el portavoz del grupo nacionalistas vascos tampoco esta enmienda de transacción hablaba inicialmente de informe de visita previa sino que hablaba de preauditoría término por cierto que usted señor consejero fue el primero en utilizar y que también está recogido

respuestas escritas que dio a este grupo parlamentario por lo tanto hemos incorporado también esos cambios a propuesta del grupo nacionalistas vascos incumplimientos recomendaciones en lugar de deficiencias informe de visita previa en lugar de preauditoría e incluso hemos modificado la parte final de ese primer punto en lugar de hablar de lograr la acreditación durante el primer trimestre de dos mil catorce hemos incorporado también la propuesta del grupo nacionalistas vascos pueda así con garantías dicha acreditación durante el primer trimestre de dos mil catorce por lo tanto es una transaccional que ha sido acordada entre el partido popular grupo socialista partido nacionalista vasco y upyd el señor orbegozo ha tenido que realizar alguna llamada urgente a media mañana para

esta transaccional es también la suya pueden si no quieren firmarla ya al menos votarla no sabemos si saldrá en caso de que

demostrado el acuerdo entre una mayoría de grupos para que el departamento tome todas las medidas necesarias para que este instituto pueda

cumplir y pueda ser acreditado en el caso de que no salga aprobada upyd y el resto de grupos espero

del señor consejero y también de la directora de investigación innovación sanitaria y del director de biocruces en la comisión correspondiente para que cuanto antes explique lo que esta enmienda transaccional pide ya digo que aquella interpelación fue la interpelación constructiva que presentamos cuando tuvimos conocimiento

como instituto de investigación fue sorprendente la respuesta

que debería ya comprender un año después de haber asumido su cargo que los grupos parlamentarios estamos básicamente para controlar la acción del gobierno aquella

por el propio consejero fue realizada en fecha once de octubre de dos mil trece y como digo recogía una serie de deficiencias obviamente no insalvables

que impedían que el instituto pudiera recibir la certificación esta pre auditoría esta visita hablaba de que la propuesta no dota al centro de personalidad jurídica propia

de financiación básica hablaba de que el modelo de biocruces ideado no es autónomo para gestionar sus ensayos clínicos o proyectos de investigación

económica y organizativa varios de los puntos más cuestionados eran su gestión económica y su situación jurídica

decía que las carencias en la información aportada alcanza incluso

o el cierre económico previsto para dos mil trece hablaba de que biocruces carece de la personalidad jurídica propia que le dote de una autonomía suficiente

a lo requerido para optar a una acreditación de excelencia tampoco queda bien definida la función y aportación de las distintas instituciones que conforman biocruces biocruces carece de director científico biocruces no ha remitido decía el plan estratégico al comité científico externo para que lo evalúe no se le han remitido las memorias científicas económica y de gestión una serie de incumplimientos que deben ser corregidos y por lo tanto este es nuestro deseo que ustedes corrijan cuanto antes estos incumplimientos

llegó a señalar que el instituto biocruces obtendría la acreditación durante el año dos mil trece no ha sido así ni siquiera dijo que presentarían la solicitud dijo expresamente que obtendría la acreditación podemos recordar también que el propio portavoz del grupo nacionalistas vascos el dieciocho de abril de dos mil trece

instamos al consejero a que ponga toda la carne en el asador para que este mismo año el instituto pueda acreditarse como centro de investigación sanitaria estamos ya en dos mil catorce podemos recordar también que el partido nacionalista vasco y eh bildu firmaron una transaccional

en cuyo tercer punto literalmente se pedía al gobierno a que se comprometa a seguir impulsando la adopción de todas las medidas necesarias al objeto de poder cumplir

para obtener la acreditación como instituto de investigación sanitaria durante este año dos mil trece así decía la transaccional que eh bildu y el partido nacionalista vasco

del propio gobierno y además podemos recordar y podemos criticar también que el consejero

cosa que no entendemos por qué sino que incluso lo ocultó a los investigadores

y retrasó cuanto pudo su entrega a los grupos parlamentarios retrasó usted cuanto pudo la entrega de este informe a los grupos parlamentarios y pienso sinceramente que estos no son modos de actuar por tanto ha habido incumplimientos y retrasos y al menos los incumplimientos deben corregirse y esto es lo que esta transaccional finalmente firmada pretende que se cumplan

que la acreditación es condición necesaria para obtener financiación y poder desarrollar proyectos de investigación que situarían a nuestra comunidad a la vanguardia de la investigación

y por eso es tan importante que una mayoría de parlamentarios voten a favor de la transaccional que hemos firmado nada más y muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

dugu gaur kezkatuta gaudela eta esango dizuegu zergatik el treinta de septiembre de dos mil trece

y el gerente del hospital de cruces el señor rabanal en esa comisión nos aportaron datos sobre los

persiguiendo un fin fundamental la acreditación por parte del instituto

la firma del convenio con la upv que además de aportar personal investigador para la realización de proyectos proporciona acceso a infraestructuras complementarias y la citada cronología terminaba con un hito

la pre auditoría de biocruces el once de octubre nos aseguró

correcta y que se estaban ajustando a los plazos estimados durante todo el proceso la acreditación el treinta de septiembre nos dijeron que estaría lista para principios de dos mil catorce seguramente estaremos todos los grupos de acuerdo con el hecho de que la pre auditoría es un paso muy importante

de la relevancia y el reconocimiento esperado y que a su vez permitiría acceder a la financiación concreta para materializar los planes de futuro

al informe de pre auditoría el once de octubre saiatu gara testuingurua kokatzen eta argi dago ibilbide horretan gu beti

aurretiko bisitaren txostena garrantzitsua da oso el contenido del informe del once de octubre

en los siguientes cumplimientos si se satisfacen los estándares de excelencia de la investigación si existen incumplimientos en el articulado de la guía de evaluación en definitiva lo que se pretende con la visita previa preauditoría o lo que finalmente haya sido es orientar a biocruces en el proceso iniciado

en ese documento aparecen hasta diez incidencias sobre la falta de documentación y de informes para dar curso a la solicitud de apertura del procedimiento de acreditación

apreciaciones sobre la estructura jurídica y organizativa también se señala que no se ha podido constatar el nombramiento del director científico de biocruces

se adjuntan apreciaciones sobre el personal equipos científicos recursos de todo tipo sobre medidas de análisis de mejora por ejemplo

y termina concluyendo que una vez vistas las deficiencias

arduradunak eta haiek eman behar dizkigute azalpen guztiak señor maneiro la comparecencia de estas tres personas la pedimos nuestro grupo

pero el segundo punto las tres comparecencias somos el único grupo

biocrucesentzat decía que en el partido popular también estamos

en relación a las conclusiones del informe en relación a la visita realizada previo y necesario para su acreditación o el informe de preauditoría tal y como ha sido también calificada esa visita por el propio consejero y por la propia directora de innovación e investigación sanitaria en el parlamento vasco el real decreto trescientos treinta y nueve barra dos mil cuatro de veintisiete de febrero establece claramente cuáles son los requisitos

de investigación como el que nos ocupa el instituto biocruces para obtener la acreditación necesaria tal y como señaló la propia directora

de septiembre a la que ya se ha hecho referencia aquí el objetivo último de un instituto como biocruces un instituto de investigación sanitaria realmente es contar con un centro que contribuya con los resultados de su investigación a mejorar la práctica clínica además de generar y facilitar

de obtener la acreditación como instituto de investigación sanitaria otorgada por el carlos tercero por lo tanto objetivo la acreditación y creo que objetivo que compartimos todos los grupos con representación en esta cámara y objetivo al que tienen que ir dirigidos principalmente todos los esfuerzos

preside decía también la señora directora que esta acreditación de hecho supone o representa un sello de calidad de pertenencia a una élite de centros

que permite acceder a financiación específica por lo tanto no estamos hablando de una cuestión baladí estamos hablando de una cuestión de sumamente importancia

una de las prioridades fundamentales de este gobierno y en este caso de este departamento la propia directora repasó los pasos a seguir para conseguir

para la realización de la preauditoria que ya se hizo el dos de septiembre la autoevaluación de biocruces la preauditoría de biocruces que así la cualificó la propia directora que fue realizada el once de octubre y que se materializó en la visita en la que estamos haciendo referencia

pero viendo las conclusiones del informe de la visita o preauditoría la auditoria no ha sido posible realizarla en diciembre y también se nos dijo que

viendo que la auditoría se realizaría en diciembre se obtendría la acreditación a principios de dos mil catorce una vez elaborado el informe

ya se ha hecho referencia aquí a las conclusiones del informe y por lo tanto de la visita de la preauditoría no me voy a detener

en este informe se habla claramente de que existen incumplimientos de que hay que intensificar

de que hay que orientar algunas cuestiones

puntos nos parece llamativo el aspecto relacionado con el vínculo jurídico que se señala que el vínculo jurídico que se aporta no satisface las condiciones establecidas en el real decreto

debe aportarse más documentación en relación a la estructura organizativa y estructura única de gestión se habla de que el convenio que da origen a biocruces no se ajusta en su articulado a lo requerido para concurrir a la acreditación

contrastado no se ha podido contrastar la adscripción del personal las instalaciones y equipamientos científicos

no se ha podido constatar el nombramiento del director científico cuestión que también ha sido tratada en este parlamento y que dio lugar también a un debate

se habla también de que no se puede constatar el porcentaje de profesores asociados se habla también en cuanto a recursos económicos que debe aportarse el presupuesto dos mil catorce al menos el borrador junto a la documentación acreditativa del cierre del dos mil trece sí que nos ha llamado la atención este punto porque viendo que

contemplaba una partida específica para biocruces

hubiera aceptado la enmienda del partido popular creo que eran dos millónes doscientos mil euros y la enmienda del partido popular era uno millón de euros

para acometer por ejemplo el edificio que va a ser necesario construir y que usted mismo y la propia directora de innovación

así nos lo dijeron en la comisión correspondiente por lo tanto vemos con preocupación

los pasos descritos por la propia directora de investigación que pensaba que la auditoría se iba a realizar en el mes de

la acreditación a espera lógicamente de ese informe final tampoco se ha cumplido ese punto número tres

firmado en una enmienda de transacción entre eh bildu y el partido nacionalista

en el que se comprometía o se instaba al gobierno a seguir impulsando la adopción de todas las medidas necesarias

no se ha cumplido ni los acuerdos en esta cámara suscritos por el partido

ni tampoco se han cumplido los compromisos adquiridos por usted mismo y por la propia directora como digo explicados en una comisión realizada

se decía o se señalaba la necesidad de construir un nuevo edificio a medio largo plazo

la no posibilidad de crecimiento de los mismos y por lo tanto hablamos de que la construcción del edificio

no es necesaria para la acreditación sí va a ser indispensable para el futuro

a principios del año pasado que en la situación económica actual el proyecto del nuevo edificio no era factible que los ajustes

pero viendo la necesidad de construir ese edificio

proyecto de reflexión ustedes tendrán que realizar los esfuerzos económicos y ya lamento que rechazaran esa enmienda del partido popular que incrementaba esa partida inicial

en uno millón más el nuevo gobierno decidió revisar este proyecto

y también se ha dicho que la construcción del edificio tendría lugar una vez obtenida la acreditación pero es que

pues no están saliendo muy bien o no están saliendo según parece lo previsto y la propia previsión que tenía el propio ejecutivo

también conviene recordar la dimisión de la dirección científica el pasado doce de abril cuando decían que consideraban que biocruces carece de un apoyo mínimo del departamento de salud

por lo tanto y voy concluyendo señor consejero vemos con preocupación

vemos con preocupación las conclusiones del informe de la visita o preauditoria como ustedes lo calificaron en el que se constatan claros incumplimientos que hay que subsanar para

ser así y vemos con preocupación en definitiva que se retrase la posibilidad de obtener la acreditación en el menor tiempo

de este año en definitiva es importante que se avance en este proyecto desde luego para nosotros un proyecto estratégico y por eso veíamos la necesidad de plantear deberes

presentamos una enmienda de transacción concreta en la que se hacía referencia subsanar los incumplimientos o deficiencias detectadas para poder cumplir los requisitos establecidos en el real decreto citado para obtener la acreditación nosotros también consideramos como usted señor consejero

es el más idóneo estamos como decía hablando de una

no va a ser posible un acuerdo en esta cámara hoy a tenor de los posicionamientos de los distintos grupos yo lamento que no sea así lamento ademá s que el partido nacionalista vasco en concreto pues firmara un acuerdo con eh bildu hace

que no se ha cumplido y lamento que haya perdido la oportunidad

se pueda llevar acabo o se puedan cumplir esos pasos preceptivos para conseguir esa acreditación no obstante nosotros también

del consejero para que nos dé cuenta de qué pasos están realizando para subsanar esas deficiencias

egun on denoi señorías estamos hoy aquí por la evolución negativa que el gobierno y el departamento de salud y consumo

al instituto de investigación biocruces en el proceso de acreditación como se ha dicho antes el venir aquí con un espíritu constructivo no impide ver la realidad y el grupo socialista somos muy críticos con la actuación del departamento de salud y consumo desde el consejero a la directora de investigación e innovación sanitaria

en su actuación hacia la acreditación del instituto de investigación sanitaria biocruces lo mejor que se puede decir es que hemos perdido un año por la irresponsabilidad

en primer lugar desde el inicio de la legislatura empiezan por criticar el edificio luego el proyecto científico cesan a todo el mundo

y se ponen a reflexionar estupendo una decisión maravillosa liquidan todo lo que existía y se ponen a reflexionar

hacen efectivo el cese de la dirección científica existente hasta ese momento

que este equipo científico tenía ya un proyecto que estaba muy bien visto con

al conocer el proyecto científico ya le concedieron diez millónes y medio

eso significa que había un proyecto científico y un proyecto de edificio en aras a la acreditación del hospital que ustedes se lo cargaron de un plumazo

era un corte inglés como usted señor consejero dijo aquí despectivamente claro que como el parlamento estaba preocupado desde el minuto uno de la legislatura

y hacer como que hacía como que hacía a la vista de los resultados porque claro

el treinta de septiembre comparece usted voluntariamente en comisión de salud con todo el equipo encargado de la acreditación de biocruces

etcétera etcétera por cierto con unas declaraciones absolutamente triunfalistas

pero la pregunta es habían leído el real decreto trescientos treinta y nueve barra dos mil cuatro en el que se especificaba los requisitos que había que cumplir para conseguir la acreditación lo que sí que le

que hicieron un acuerdo con la upv lo que no dice usted es que ese acuerdo ya estaba preparado por el equipo anterior estaba preparado el acuerdo con la upv por el equipo anterior

como digo en aquella comparecencia habían conseguido colaboradores expertísimos tanto internamente de osakidetza como del departamento como externos

el convenio de colaboración con la upv en fin todo estaba ya tan hecho que incluso adelantaron fechas para la acreditación

a una visita que es previa a la auditoria por cierto

erróneamente como me contesta usted por escrito por utilizar el término pre auditoría le recuerdo que usted y todo su departamento fueron quienes primero

el término pre auditoría si no los parlamentarios hubiéramos utilizado el término visita previa a la auditoria de acreditación

que no vuelva a intentar corregir los términos que utilizamos los parlamentarios sobre todo si son seguimiento de sus propias terminologías

el proyecto científico muy importante la estructura organizativa muy importante y el nuevo edificio también aceptaron que era necesario todo esto para el camino de la acreditación pero claro quince días después mejor dicho once días después viene la realidad y el informe de los auditores de la carlos tercero

no se sabe si es que no habían leído el decreto o no sabían qué requisitos había que cumplir

son bastante largos y bastantes importantes menos mal que era el trabajo estupendísimo que usted señaló en la comisión que había hecho todo el equipo

las gracias porque habían hecho un trabajo maravilloso pero claro aquí ya le han leído los incumplimientos que yo

lo que sí le quiero decir es que en la interpelación vuelve usted a decir

que el informe y eso es un eufemismo es solo un mero paso

y que la principal característica del proceso es el dinamismo claro

que es ese movimiento continuo no es en círculo verdad como se ha dicho aquí antes en alguna otra ocasión en rotonda sino que persigue un fin entonces el dinamismo sí que es importante pero hace falta que persiga ese fin

no sabemos cómo estamos hoy lo que sí sabemos es que carlos tercero dice que no procede realizar la auditoría para la acreditación hasta que no se hayan salvado

entonces yo no le voy a calificar el incumplimiento de otros acuerdos parlamentarios previos

en cuestión la palabra del lehendakari usted sabe que el lehendakari ha firmado un acuerdo con el partido socialista en el cual se compromete personalmente a cumplir todos los términos del acuerdo y en el acuerdo como usted sabe está la acreditación

y la construcción del nuevo edificio por tanto lo que sí se le puede exigir es que no ponga usted en cuestión la palabra del lehendakari no ponga usted en cuestión la palabra de gasco y por tanto nuestro grupo

porque en este momento y dados los incumplimientos previos no sabemos cómo está la situación peligra la financiación concedida

aquellos diez millónes y medio que se daban para la construcción del edificio con un periodo de carencia de tres años

también concedidos para la construcción del edificio cómo está la situación

o en la subsanación de deficiencias contenidas en el informe de los auditores del carlos tercero del once de octubre por eso creo yo que es importante

que los parlamentarios estamos comprometidos con la investigación en euskadi desde el primer minuto porque creemos no solo es la defensa del instituto biocruces creemos que la investigación y la innovación y en este caso la sanitaria son una herramienta fundamental para la construcción de futuro de euskadi por eso estamos empeñados en la investigación por eso estamos empeñados en el instituto de investigación biocruces y

y han pasado tres años desde que biodonostia obtuvo la acreditación y ha pasado toda una legislatura la del lehendakari

con el apoyo de su socio preferente partido popular sin que biocruces

y por lo que hemos conocido sin que se pusiese demasiado empeño en conseguirlo a no ser que alguien pensara que con presentar un proyecto para construir un nuevo edificio

que algunos grupos parlamentarios acusaran al departamento de salud y a este grupo parlamentario de nada más y nada menos que de cargarse el que estaba llamado a ser el referente en materia de investigación sanitaria de euskadi del mundo como si la actividad investigadora que se ha venido desarrollando en el hospital de cruces y su futuro

de la construcción o no de un edificio y eso cuando en ningún momento ni el consejero de salud ni este grupo parlamentario han afirmado

de nuevas infraestructuras adecuadas al proyecto real y en esas estábamos cuando hace un par de meses tuvimos conocimiento de que un grupo de auditores

se había desplazado a biocruces y había emitido un informe

extraprocedimental que habían realizado al instituto y casualmente dicho informe que

y algunos lo han detallado pero que todos han omitido un dato muy importante es que ese informe afirmaba que biocruces

necesarios para poder acreditarse es decir

tal y como se obcecaron en defender algunos grupos y todavía siguen empecinados algunos y además también hace mención expresa de la calidad de la investigación realizada en el hospital

etcétera etcétera y es cierto como se ha dicho

sobre aspectos en los que debería intensificar sus actuaciones antes de concurrir a la acreditación

no menciona en ningún momento la necesidad o el requisito imprescindible de construir

y lo cierto es que es muy difícil de entender que si la cuestión del edificio no era imprescindible para la acreditación si biodonostia inició su andadura a la par que biocruces y este último aún no se ha acreditado

que orientara al instituto en el camino de la acreditación si estaba todo hecho como ha señalado la señora roncal y ni siquiera hubo una visita previa a qué se dedicaron los responsables del instituto

porque bien es cierto que el informe de la visita previa de octubre de dos mil trece

algunas de ellas sobre aspectos imprescindibles para optar a la acreditación imprescindibles porque son básicas tal y como ha enumerado también el señor maneiro como por ejemplo

no existía ningún convenio con la upv dotar a biocruces de entidad jurídica propia y unos estatutos sociales propios tampoco existían

presentar memorias o documentación de la actividad de los últimos cinco años etcétera etcétera etcétera que no existía nada de eso y luego pregunta por qué no se había leído el real decreto trescientos treinta y nueve barra dos mil cuatro

no se acometió ninguna de esas actuaciones que resultan o las que se califican como imprescindibles

ha tenido que empezar prácticamente de cero seguramente

en la legislatura anterior de poder realizar una visita previa habríamos podido conocer realmente

no era la falta de un nuevo edificio aspectos que finalmente ha sido posible conocer gracias a la labor del nuevo equipo

del real decreto que hemos citado biocruces tiene todo el apoyo del departamento de salud y de los restantes miembros del consejo rector que lo componen osakidetza y desde hace unos meses la universidad del país vasco cosa que no ocurría

desde el inicio de la legislatura el departamento de salud del gobierno vasco ha ido tomando todas aquellas medidas necesarias para que biocruces pueda conseguir la acreditación otorgada por el instituto carlos tercero como instituto de investigación